muchas gracias presidenta señorías doy la bienvenida

del colectivo de inspectores y encuestadores del eustat afectados por la iniciativa que traemos esta tarde al pleno hoy con nosotros bienvenidos al pleno hoy en esta iniciativa tenemos que hablar

arrastrando desde hace veinticinco años el colectivo de trabajadores que presta servicios como

vamos a hablar de precariedad en la administración pública vamos a hablar de mujeres que lo sufren especialmente vamos a hablar de las condiciones en las que acceden a su jubilación y vamos a hablar del diferente trato que reciben

y de las enormes dificultades que tiene este gobierno con los empleados públicos de todo esto va este debate esta situación se inicia con la ley de función pública vasca del año ochenta y nueve

públicas vascas la puesta en marcha de un modelo que diera cobertura a las políticas de empleo público de cada una de ellas y que en el ámbito que hoy nos ocupa abría la vía para la realización de la contratación laboral para de estadística desde hace veinticinco años este servicio ha venido realizándose para el eustat por este personal alrededor de noventa y cinco personas concatenando desde entonces contrataciones temporales con una duración media por cada contrato de tres a seis meses y llegando

año varios contratos temporales al iniciar el año estas trabajadoras y trabajadores no saben cuántos meses trabajarán saben el global

por todo el colectivo durante todo el año pero no saben para cuáles serán llamados unos y otros cada servicio para el que son contratados lo saben

el colectivo afectado está compuesto mayoritariamente además por mujeres con una edad media de unos cincuenta y cinco años colectivo altamente castigado

y por lo que de no regularse también lo antes posible

cuando lleguen a su jubilación

a pesar de llevar prestando servicios desde hace tanto tiempo y de realizar tareas siempre con el mismo objeto aunque con diferentes nombres de contratos

en relación a este colectivo al no variar la situación en este tiempo los afectados iniciaron demandas contra el eustat instituto vasco de estadística durante los años dos mil nueve dos mil once en la actualidad

que afectan a unas noventa y cinco personas ya que algunos de ellos han obtenido sentencias tanto para el puesto de trabajo de inspectores como para el de encuestadores y donde se les reconoce la condición de indefinidos discontinuos a todos ellos estas sentencias obligan a la creación de la relación de puestos

como he dicho esta rpt todavía no se ha realizado sin embargo el año pasado dos meses antes de las elecciones municipales el consejero de administración pública y justicia el señor erkoreka

de lanbide como la rpt del eustat la rpt de lanbide ya ha finalizado como todos sabemos y aprobado sin embargo la rpt del eustat

solo se mantuvo una reunión a principios del año pasado y después de nuevo paralización total

en acuerdo de mesa general el gobierno se comprometió en su día a recuperar o revertir a lo público la externalización de contratos de las operaciones estadísticas del eustat además

contando para ello con el visto bueno del eustat en la única reunión que se realizó al inicio del dos mil quince que se llevó a cabo para la elaboración de la rpt

los doce meses del año cuarenta plazas para seis meses y treinta y nueve plazas cuatro meses propuesta fue rechazada de plano por la representación sindical y los trabajadores afectados al no haberse cumplido todavía

general para prestar servicios en el eustat donde se firmó el incluir las operaciones estadísticas actualmente privatizadas en el estudio de reversibilidad

la situación es compleja dado que viene arrastrándose desde hace muchos años veinticinco años mi grupo parlamentario

pero insisto en dos mil once se puso sobre la mesa el acuerdo regulador para poder al menos encauzar los problemas de los trabajadores del eustat

por eso digo por qué a unos trabajadores se les ofrece unas soluciones y se les niega a los del eustat eso es lo que ocurre ahora en el dos mil dieciséis lo que planteamos es que si existe el problema si el gobierno ha presentado soluciones para otros casos como ocurrió en el caso de lanbide por qué no se plantea para el eustat porque unos prestan un servicio de atención directa a la ciudadanía y los otros no

y cualquier protesta también se considera que puede tener menos repercusión o porque el empleo femenino tiene

en este caso hay un problema hay que buscar solución vamos a atajarlo cuanto antes y para ello es imprescindible a juicio de mi grupo parlamentario los socialistas vascos que se aplique el acuerdo de febrero del dos mil once en dicho acuerdo

de un estudio organizativo donde se tenía que valorar el dimensionamiento necesario para asumir con personal fijo el desempeño de la actividad ordinaria del eustat este estudio organizativo no se ha presentado en ningún momento para la representación sindical ni a los trabajadores afectados más tarde de firmarse el acuerdo en febrero del dos mil once la elaboración del mismo es esencial para poder regularizar la situación actual del colectivo

actualmente externalizados se podría contratar

por eso solo se puede conseguir si se quiere hacer

hay que tener en cuenta que el colectivo aunque hace un año eran como he señalado con anterioridad unas noventa y cinco personas en la actualidad estará en torno

ochenta y cinco personas por causas de fallecimiento por jubilaciones etcétera el colectivo ha disminuido

en estos momentos una rpt teniendo en cuenta el trabajo real realizado durante años que conlleva una consolidación de empleo realizado por los afectados mi grupo parlamentario le pide al consejero de administración pública y justicia que inicie ya seriamente el proceso para solucionar esta situación

no lo ha hecho se ha perdido toda la legislatura sin haber hecho nada hasta ahora y eso que anunció antes de la campaña electoral de las municipales y forales

emprender el estudio de organización la elaboración de ese estudio de organización es importante y determinará claramente la carga de trabajo existente una vez evaluado qué operaciones se reviertan y que están privatizadas actualmente para contratar a jornada completa al colectivo afectado

de todo el colectivo afectado y es por ello por lo que defiendo la propuesta presentada por mi grupo parlamentario los socialistas vascos que se recoge en la transaccional

dado que dentro de la misma se encuentran todos los pasos a dar y que se deberían de realizar ya y todos estos pasos se recogen en esta

se tienen que realizar sin necesidad de esperar más con independencia de la aprobación del proyecto

actualmente en tramitación dentro del parlamento vasco y por ello defiendo nuestra iniciativa como he señalado en la cual se insta al parlamento vasco a que se modifiquen los planteamientos actualmente presentados en la propuesta de rpt

a la representación sindical y presente una nueva rpt antes del treinta de junio del dos mil dieciséis en la que todos los puestos que se recojan para el personal afectado dentro de la misma sean a jornada completa durante todo el año

que en un principio era el treinta y uno de diciembre de dos mil quince que lógicamente

en segundo lugar a que realice con carácter previo a la elaboración de la nueva rpt un estudio organizativo donde se determine el dimensionamiento necesario para asumir para el personal fijo el desempeño de la actividad ordinaria del eustat que garantice

afectado con el fin de saber cual sería la reversión necesaria de externalizaciones para ello en tercer lugar

tal como se ha venido realizando en otras relaciones de puestos de trabajo

de consolidación el acceso a los puestos convocados y por último que el gobierno vasco cumpla los acuerdos y convenios

con el fin de resolver definitivamente la situación de precariedad que padecen los trabajadores afectados desde hace veinticinco años no se puede retrasar más es de justicia y que el estudio organizativo la creación de la comisión técnica la elaboración de la rpt

antes de finalizar la legislatura y antes del treinta de junio de este año para luego poder sacar la oferta pública de empleo hoy espero

sea aprobada y agradezco al grupo parlamentario eh bildu la predisposición a firmar desde el primer momento la transacción que hoy presentamos aquí y también al partido popular

momento desde el principio de presentación de esta iniciativa que estaban completamente de acuerdo con la misma y que por ello no iban a presentar enmienda a la totalidad a la misma es lo que yo creo que hay que hacer y por tanto

con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta cámara para que salga

esaten dena erdaraz esto es que las sentencias reconocían que son

pero discontinuos es decir tal y como recoge el estatuto de los trabajadores se trata de contratos indefinidos

estables pero discontinuos en el tiempo por lo tanto desde el año dos mil nueve ya se conocían estas sentencias y la necesidad de recoger esas plazas en una rpt

sin embargo desde el año dos mil nueve no se tomó ninguna decisión respecto a la creación de una rpt

como se había venido haciendo hasta ahora de hecho en febrero de dos mil once

y los sindicatos ela y comisiones obreras firmaron un acuerdo para regular los llamamientos de todas esas personas declaradas indefinidas discontinuas en el eustat en dicho acuerdo de dos mil once

asumieron la discontinuidad y se limitaron a adoptar un sistema

también en dicho documento además de regular los llamamientos se acordó elaborar un estudio organizativo para determinar el dimensionamiento necesario para asumir

la actividad ordinaria de eustat y en tercer lugar se acordó incluir las actividades externalizadas en el estudio de reversibilidad de las externalizaciones pactado en el momento actualmente

gure zuzenketa babesteko asmoa berresten dugu lo que nosotros planteamos es

dos mil once que el gobierno vasco realice un nuevo estudio organizativo para poder analizar las necesidades de personal de eustat

la actividad ordinaria que permita revertir al máximo las externalizaciones

negocien y acuerden en la mesa sectorial la rpt que se deba crear

se realice dentro del proceso de consolidación de empleo temporal que se recoge en la ley de empleo público vasco es decir estudio organizativo

y cobertura de puestos en procesos de consolidación por lo tanto nosotros también estamos de acuerdo en la necesidad de realizar

para poder hacer un análisis objetivo de las necesidades reales de personal en eustat al contrario creemos que sin un análisis objetivo que lo sustente

durante todo el año en ese sentido entendemos que hay que hacer un nuevo estudio organizativo que tenga en cuenta también las externalizaciones

exigir que se contrate a todas las personas con jornada completa todo el año en el primer punto

el dimensionamiento necesario para examinar la actividad ordinaria con personal fijo beraz

gracias señora presidenta buenas tardes a todos y buenas tardes también a los trabajadores del eustat aquí presentes

referencia ya se han mencionado aquí efectivamente el instituto vasco de estadística fue creado hace treinta años y

en segundo lugar la recogida de información y en tercer lugar la explotación y difusión de los datos

de información se realiza por personal laboral y esto plantea la primera cuestión y es por qué

esos trabajos se realizan por personal laboral y no por personal funcionario por qué desde el primer momento se hace a través de contratos temporales una serie de actuaciones que tenían carácter estructural y que se realizaban durante todos los años es verdad y nosotros lo podemos reconocer que puede haber necesidades extraordinarias

de temporal pero lo que no es razonable es que desde el principio esas tareas sean encargadas a personas cuyos contratos oscilan siempre entre los dos y los seis meses

esta relación de puestos de trabajo la verdad es que los planes estadísticos se han ido aumentando las operaciones estadísticas aumentando y sin embargo eso no iba acompasado de regularizar la situación laboral de esos trabajadores y eso

recurrir a servicios externos subcontratados una partida que además se ha ido incrementando año

subcontratando más servicios como se ha dicho aquí la situación afecta

en su mayoría mujeres y el hecho de que sean contratos temporales influye además de en su sueldo influye como se ha dicho aquí también jubilación durante los años dos mil ocho y dos mil nueve tuvieron que acudir a los tribunales como se ha dicho aquí para modificar su situación y los tribunales son los que le dan la razón y

le consideran fijos porque estaban realizando labores estructurales

bastante aquí y por qué les consideran discontinuos les consideran discontinuos porque algunas de las actividades que deberían de realizar se realizan a través de servicios externos

si realmente se hubiera producido un reparto de esa carga de trabajo durante todo el año y se pudiera haber hecho

esa carga durante todo el año el tribunal vasco de cuentas públicas también consideró que e eustat incumplía la normativa vigente sobre contratación

consideradas por los tribunales como fijos discontinuos por su carácter reiterado y que por ello era por lo que se habían producido estas sentencias favorables

lo que no vale tampoco señor orbegozo es que ahora usted aluda que esto se tuve que hacer en gobierno de patxi lópez y no se hizo porque mire hay un refrán español muy castizo que es unos por otros la casa sin barrer

solución ahora y la verdad es que si se quiere se puede dar solución pero la solución evidentemente no está en

a ciento ochenta días de contratación por año y treinta y nueve plazas ciento veinte días de contratación por año y cuál es la justificación que ustedes dan que no hay carga de trabajo durante todo el año

la cuestión si se revierten las actuaciones que en este momento están externalizadas probablemente sí hubiera carga de trabajo durante todo el año y qué es lo que se tendría que hacer el estudio que se tendría que hacer ver cómo se distribuye a lo largo del año

yo lo he hablado con usted puede haber momentos puntales en los que se tengan que realizar determinadas encuestas en un periodo muy determinado del año pero la recogida de información no siempre es así la recogida de información se puede distribuir a lo largo del año

se podrían hacer contratos de todo el año para todos esos trabajadores sabe de qué es lo que estamos hablando de que haya voluntad

este gobierno tiene que poner sobre la mesa y se lo tiene que decir a los trabajadores

o no existe no poner excusas de que es que no hay trabajo cuando si se revierten

se trata de voluntad se trata de ver realmente de revertir esas operaciones como le digo que están externalizadas de hacer

esas operaciones durante todo el año y de que exista sobre todo y con carácter previo esa voluntad de que esos contratos que en este momento son temporales van a pasar a ser fijos porque los tribunales han dicho que tienen que ser fijos pero que además pasen a ser todos ellos no solamente una tercera parte todos ellos pasen a ocupar todas las jornadas del año y además con unos sueldos que tampoco es que sean que por eso precisamente compensa la reversión de las actuaciones de eso es lo único que se trata de lo único el resto es marear la

vamos a ver señor

yo he señalado en mi primera intervención que esto tiene su origen ya con la ley de función pública

estaban ustedes en el gobierno por otra parte

le dejamos ya los mimbres preparados con la firma del convenio y el acuerdo regulador del diecisiete de febrero del dos mil once del llamamiento al personal de la administración general que prestaba servicios en el eustat donde se recogía ese acuerdo de reversibilidad de las externalizaciones que se realizaban para los trabajos de estadística en el eustat

con las sentencias en las que se les reconocía como indefinidos discontinuos

de estadística los que encontrándose en las mismas situaciones con anterioridad a lo que ocurrió aquí hicieron sus reclamaciones y se reconoció exactamente igual que a los trabajadores aquí como indefinidos discontinuos

aquí lógicamente se hicieron las demandas y se ganaron porque era lo lógico y eso se produjo durante dos mil nueve y el dos mil once pero ustedes cuentan ya

tres años sin hacer absolutamente nada y además

hace un año que iniciaban la rpt de los trabajadores del eustat

hasta el día de hoy hasta que llegamos a este pleno porque esa es la situación en la que estamos ahora

pero querer es poder como también hemos manifestado los distintos representantes de los distintos partidos

no es sencillo pero hay que sentarse a realizar ese estudio organizativo

todo ese trabajo para que esos inspectores y esos encuestadores del eustat puedan tener

el año y que también se evalúe dentro de la comisión técnica como se ha hecho en otras relaciones de puestos de trabajo y con eso con todo ese estudio organizar la rpt de una forma correcta que resuelva

y la situación de precariedad que tienen estos trabajadores y estas trabajadoras desde hace veinticinco años

esta situación hay que estudiarlo simplemente hay que hacer ese estudio pónganse ya a realizarlo están perdiendo mucho tiempo en el camino

querer es poder ustedes pueden hacerlo y tienen la obligación de hacerlo

los que están ahora en el gobierno nosotros les pedimos que hagan el esfuerzo es fácil si se pone aunque

desde luego no se va a resolver nunca el conflicto creo que ha llegado el momento de ponerse

antes del treinta de junio de este año nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

incluir las operaciones estadísticas actualmente privatizadas en despido de reversibilidad de las externalizaciones pactado en el acuerdo actualmente

por un tema también seguramente de optimización

públicos en el informe realizado por la función pública

se decía que el coste de la rpt que se proponía

era de dos millónes ciento ocho mil euros y sin embargo

operaciones por valor de tres millónes se han externalizado en estos dos últimos años entonces

pues seguramente incluso es más rentable para la administración

contratar a los trabajadores a jornada completa para todo el año

que no tiene que ser este el motivo pero que nosotros encima vemos que seguramente

al presupuesto seguramente también sería más

y bueno para terminar pedir al resto de grupos

esta propuesta esta enmienda y bueno el gobierno en caso de que salga adelante

a esta petición y que de una vez se pueda solucionar

que vienen viendo estos trabajadores desde hace un montón de años eskerrik asko

atender preferentemente con medios propios los servicios necesarios para desarrollar su actividad hori egiten du eta guk horrela

ninguna nueva actividad existente que ahora no esté subcontratada

zegoena baino gero esaten du revisar todas las externalizaciones existentes para velar que cumplen la normativa poner en marcha mecanismos para evitar la cesión ilegal de trabajadores

y ahí se dice que el personal encuestador e inspector son trabajadores indefinidos discontinuos

dice que son fijos pero discontinuos no se dice nada de jornada completa todo el año

el psoe como he dicho antes si los sindicatos firmantes en dos mil once

la discontinuidad y firma de un sistema para ejecutar las sentencias por qué no se trató en ese momento nada de que las jornadas tenían que ser al cien por ciento

por otro lado los contratos laborales temporales se han utilizado con normalidad por todas las administraciones públicas y sí es cierto que en el dos mil once

pero bueno hasta el dos mil nueve se han utilizado en todas las administraciones públicas con normalidad de hecho se siguen utilizando

es prácticamente la misma situación o sea es gente que hace una serie de trabajos muy puntuales y en unas fechas muy concretas en este caso estamos ante una situación parecida

la representante del partido popular que no es razonable pues es cierto es una opinión

y la podemos compartir incluso pero es que hasta el dos mil nueve no había nadie que dijera algo o sea nadie había dicho

fuera en contra de la ley por lo tanto los fijos discontinuos la interpretación que usted hace

muy imaginativa pero no es lo que se dice en las sentencias y la solución pues sí está en realizar el estudio objetivo lo que pasa es que ese estudio objetivo tiene que ser anterior a afirmar a que todos los trabajadores que ahora mismo están en esta situación

por lo tanto nosotros lo que pedíamos precisamente con ese estudio objetivo es eso que se haga un análisis

y buscar la solución y probablemente como usted decía pues puede ser que las reversiones

ese porcentaje al que se refería usted

señor orbegozo imaginativo no no es una solución imaginativa fijos discontinuos por qué

yo recuerdo perfectamente que la diputación foral de bizkaia

durante todos los años para que hiciesen las declaraciones de la renta

y eran siempre los mismos qué pasó que al final

claro que eran discontinuos porque eran tres meses aquí por qué son discontinuos porque como una parte de la carga de trabajo la están realizando determinadas empresas

entonces solo hay trabajo por eso son discontinuos para algunos

esa es la cuestión cómo dejarían de ser discontinuos si se revierten las externalizaciones y ese trabajo

y usted dice la enmienda mire la enmienda es un no me quiero quedar fuera eso se llama en política sino me quiero quedar fuera y presento esto es eso porque con voluntad

analizar la posibilidad dentro del marco de estudio organizativo de suprimir los contratos administrativos los contratos que se tengan con las empresas digo yo que no serán

tendrán un plazo de validez una vez que termine ese plazo uno se puede plantear revertir y no seguir firmando el contrato

del eustat es así de sencillo de qué se trata de qué se trata de ver si hay voluntad de que eso no se externalice

sean todo el año todos esa es la cuestión esa es la cuestión y sino es decir aquí claramente no por qué porque es más rentable

pero en todo caso decirlo aquí no decir estudiar la posibilidad como si tuviéramos que hacer aquí no se castillos en el aire cuando no es así yo eso lo he dicho en mi intervención yo

entendía perfectamente sus reclamaciones y por eso como le dije a la señora sánchez no iba a presentar ninguna enmienda porque la iba a votar tal cual creo que

a la que se ha llegado es una enmienda que es parecida e incluso mejora la iniciativa original y la vamos a seguir votando

pero no me quiero comprometer yo solo le digo que aquí no vale

a otra administración el partido nacionalista vasco sería el primero en la pancarta sí se hacen reclamaciones en todas las administraciones
en las que estamos en la oposición y en las que apoyamos nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaitu denez

gracias de nuevo señora presidenta buenas tardes bien la verdad es que

igual que el anterior es un tema que viene de lejos y es un tema que nosotros que no se acaba de solucionar aunque nosotros mismos reconocemos que existe cierta dificultad pero que con voluntad como decía antes también creemos que se puede solucionar y adquiere importancia los contratos de los que voy a hablar de estas viviendas vencían en noviembre del año pasado como les decía este es un asunto que viene de lejos un asunto

que son cedidas al gobierno vasco para que se construyesen unas viviendas de protección oficial después de un concurso de ideas esto da lugar

entran a vivir más de mil vecinos estas viviendas son construidas por una ute

los problemas y las frustraciones porque en el folleto publicitario de dichas viviendas

ya desde el primer momento se ve que esa opción de compra ha desaparecido casi desde ese primer momento los vecinos se sienten frustrados y engañados pero se les concede

y acaban firmando un contrato de alquiler que tendría un plazo de duración de doce años ya los vecinos desde ese momento se quejan que el gobierno vasco desaparece que no les da ninguna solución ni ninguna ayuda en ese momento y que tampoco

de todo el proceso desde ese momento casi como decía viven momentos de frustración y de incertidumbre de frustración como decía porque esa posibilidad de adquisición

y sobre todo incertidumbre porque los distintos gobiernos no les acaban de dar una solución que sea definitiva a su vivienda se sienten ninguneados porque cuando van hablar con la empresa la empresa les dice que esto es un asunto del gobierno vasco

y que ellos no tienen mucho que intervenir

del que quieren salir y del que piden salir por eso como decía los vecinos casi desde el principio forman una asociación que ha ido teniendo contactos con los sucesivos departamentos de vivienda del gobierno vasco contactos pero que no les acaban de dar una solución definitiva y contactos que además con este último

que se produzcan es una asociación muy activa aunque también nos contaba el representante de la misma que

porque en cierta forma tienen temor a las consecuencias que la pertenencia a la

y es una asociación que ha logrado que los vecinos de esas viviendas estén unidos que estén cohesionados y que hayan formado un barrio

no se rompa es esa asociación realmente son los vecinos los que se han movido los que han ido obteniendo los distintos logros los pequeños logros que han podido ir consiguiendo son los vecinos los que nos dieron la documentación

un extracto de la misma fue repartido por el representante de la misma cuando en junio compareció en esta cámara

por las que han pasado gracias a las movilizaciones de los vecinos como decía se han ido pudiendo conseguir pequeños logros así a finales del dos mil diez se cumplían los doce años de arrendamiento y

año a año hasta el año dos mil veintiocho y lo que hicieron es moverse para conseguir periodos más largos

con la ute obtuvo el compromiso de un sistema de prórrogas por cinco años y que a partir de ese momento las prórrogas fuesen

sí que puede hablar con la empresa y puede conseguir avances

en noviembre del año pasado y desde aquí nos alegramos porque ayer estuve hablando con el representante de los vecinos que parece que han conseguido una prórroga por otros

este grupo presentó una interpelación al entonces consejero señor aburto para ver si el gobierno vasco se implicaba y después de reunirse con los vecinos y también con la empresa podía satisfacer las demandas que tenían los primeros ante la falta de voluntad del entonces señor consejero señor aburto acabamos presentando una moción en esta cámara moción que no pudo ser aprobada finalmente pero todo lo que este grupo dijo como defensa de esa moción fue reiterado por el representante de los vecinos de benta berri que acudió a esta cámara como le dije

este grupo lo intentó mantener al margen del debate político por ello nos reunimos con el departamento para proponerle que se reuniese tanto con la empresa como con los vecinos para darle

que es como decía cuestión de voluntad que el gobierno tenga voluntad de implicarse la enmienda del pnv del partido que apoya al gobierno señala que el gobierno vasco se reúna cuando lo soliciten los vecinos creemos que la solicitudes de los vecinos están sobre la mesa

es ya una petición esa misma comparecencia lo que él dijo allí es ya una petición de reunión como decía en esa comisión de empleo política sociales y viviendas compareció ese representante de benta berri

él mismo ya estaba pidiendo esa mediación era una petición que se le habían trasladado los vecinos y sobre todo

también conseguir una solución definitiva que no estén siempre pendientes

encima también querían que se solucionasen otra serie de cuestiones que yo planteé en esa moción y que él también reiteró en esa comisión la posibilidad de hacer permutas cuando las circunstancias así lo demanden porque hay algunos que pueden tener una necesidad de vivienda más grande o bien de cambiarse a otra más pequeña porque

y ellos lo único que quieren es que se cambie una vivienda por otra por supuesto con el cambio en su caso del alquiler pero ni tan siquiera piden porque ellos planteaban el problema de que quizás la empresa no quisiese porque tendría que volver

es que se pueda hacer esa permuta también ellos planteaban el problema de que no pueden renunciar a esa vivienda y solicitar

como tienen que estar un periodo de tiempo pues al final podrían quedarse en la calle y sin vivienda en definitiva como decía

lo que yo también expuse en este mismo pleno que es una cuestión de voluntad

que no es sencillo jurídicamente que es verdad que no es sencillo pero que si van de la mano del gobierno vasco si este media entre las dos partes los vecinos y la empresa la solución desde luego es mucho menos dificultosa por ello como decía qué es lo primero que tiene que hacer y es el primer punto que nosotros solicitamos

con los vecinos no nos consta a lo mejor el representante del partido nacionalista vasco hoy nos lo dice aquí no nos consta ya digo que ni antes de esa moción que yo defendí aquí ni antes de la comisión ni hasta este momento

una reunión con los vecinos para que estos le hayan podido hacer sus planteamientos para que estos les soliciten lo que nos solicitaron aquí que se medie con la empresa para conseguir un compromiso que dé una solución lo más definitiva posible a esos contratos tampoco para que además hable de las permutas y para que pueda hablar le pueda plantear los problemas del acceso a etxebide nosotros el texto de la proposición que traemos hoy aquí es el mismo de la moción que no pudo ser aprobada

con el que se mostró de acuerdo el representante como digo de los vecinos cuando vino a esta cámara y nosotros no hemos transado precisamente porque nosotros esta solicitud la traemos de la mano de los vecinos una solicitud que hicieron los vecinos hace mucho tiempo y que la plantearon y para

que no les abandonáramos y que fueron de la mano y por eso hemos presentado la misma porque es verdad que los tres puntos de la enmienda que presenta el partido nacionalista vasco

es una enmienda de quedar bien porque en todos los puntos pone la misma coletilla si la

qué legislación la actual si el decreto lo permite el decreto no se puede modificar no se pueden hacer determinadas excepcionalidades si lo solicitan los vecinos en todas parece que se incluye la coletilla

se quede en agua de borrajas si se está de acuerdo de verdad con intentar dar una solución

en esa comisión el texto es claro y meridiano el resto

será un intento de no quedarse fuera pero no será intentar solucionar lo que tanto tiempo

son unas demandas perfectamente asumibles en primer lugar que el parlamento vasco inste al gobierno vasco que a través de la viceconsejería de vivienda

y con la ute valorar sus demandas y planteamientos y mediar entre ellos a fin de encontrar una solución conjunta y definitiva a la situación

en segundo lugar instar al gobierno vasco a que dentro de esas soluciones

cuando hay un cambio de necesidades o circunstancias y en tercer lugar

con el fin de que puedan acceder al registro los inquilinos de las citadas viviendas de benta berri u otros arrendatarios de vivienda pública en situaciones similares

que se cumplan los requisitos socio económicos y de renta contemplados en la normativa en vigor como décimos es cuestión de voluntad de mera voluntad

el departamento de vivienda puede hacer mucho en este asunto puede implicarse para dar la solución a estas quinientos familias es lo que nosotros solicitamos es
lo que pidió como digo el representante de los vecinos en esta cámara y por ello yo les solicito su apoyo a nuestra iniciativa eskerrik asko

presidenta desde el escaño para decir que la iniciativa que se trae ya la suscribimos anteriormente la señora llanos ha expuesto el relato de este

que estamos de acuerdo con su propuesta solo que los puntos dos y tres

llevó adelante el mes de julio quiero decir que

adquisición preferente para viviendas protegidas y no protegidas en áreas de acreditada demanda está contemplado y que el futuro del parque público tiene que ser en alquiler por lo tanto vamos a apoyar la iniciativa del grupo proponente

gracias señora presidenta muy brevemente lo que pasa es que si lo hacía desde el escaño no podía verle al señor urkola la cara usted casi es más claro que

que ya me ha comentado que no podía estar aquí pero sé que va a estar atento

a este debate bueno casi fue igual de claro

lo que no fue es tan claro en la comisión porque usted lo que viene a decir

es verdad que en la comisión dijo que podía mediar pero hoy aquí ya no lo dice tan claramente porque lo que nos viene a decir es

los vecinos que no se plantea o que no debe plantearse una solución integral y que deben de plantearse vecino por vecino y siempre con el cumplimiento de la ley o sea es decir ustedes no se van a mover

de seguridad a veces para ustedes la ley es como las tablas de moisés o sea inmutables y luego en cambio otras veces

más laxas pero parece que en este caso tanto la inscripción

si es seis meses antes de la resolución del contrato significa que seis meses está fuera

no sería más razonable que se pudiera inscribir con mayor antelación

tan fácil no parece que sea no y usted lo que viene a decir es

no queda más que la aplicación de la ley y que los vecinos tengan en cuenta que hay que aplicar la ley

vamos que lo que viene a decir es que el gobierno vasco se desinhibe total y absolutamente de este asunto que los vecinos sepan que eso es

no sé si por boca del gobierno vasco o por boca del partido nacionalista vasco

lo que dicen es exclusivamente cumplimiento de la ley y que el gobierno vasco si media será entre particulares y la empresa en su caso pero desde luego no para dar una solución definitiva

no es el gobierno de las personas eso es parece ahora para el partido nacionalista vasco el valor sacrosanto de la ley por encima de cualquier otra cosa

eskertuko nizukeen bakarra da lo único que le agradecería le evito

es que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho porque si no

que usted lo que está planteando es ante toda la ciudadanía de euskadi que los vecinos de benta berri son los únicos ante los que no se tiene que aplicar la ley

planteando que los señores que están en alquiler de viviendas de protección oficial que se tienen que inscribir

lo tienen que hacer pero los de benta berri no los de benta berri pueden estar inscritos

entonces no traigamos discursos y palabras que incluso puedan convertirse en contra de los propios vecinos de benta berri aquí lo único que yo por lo menos he querido decir es que la solución conjunta que usted plantea no sé cuál es la solución si usted lo que dice es que hay que darle una solución conjunta

porque las quinientos familias que viven en benta berri cada una tiene su problemática y seguramente una solución conjunta

empeorar su situación particular con lo cual si quiere hablar de algo concreto traiga algo concreto y por favor no ponga en mi boca

posturas que no ha planteado porque a eso se le llama demagogia eskerrik asko eskerrik asko urkola jauna eztabaida amaituta